muchas gracias señora presidenta lehendakari señorías

yo mismo una interpelación al lehendakari que se sustanció el trece de junio en relación a la política de comunicación del gobierno vasco

no quiso dar explicaciones no quiso contestar lo hizo la consejera

por los pagos descubiertos los pagos con los que el gobierno vasco venía beneficiando a determinados medios de comunicación los diarios del grupo noticias

habíamos conocido varios contratos extraordinarios realizados ad hoc fuera de las campañas de publicidad institucional de los distintos departamentos contratos que regaban con decenas de miles de euros de tapadillo alrededor

con los que se beneficiaba a esos grupos de comunicación de manera extraordinaria y al margen de las campañas institucionales luego hemos sabido

que ya andan al parecer por las noticias que hemos conocido y por los datos que hemos conocido alrededor de los doscientos cincuenta mil y además hay que agradecer también a la labor

upyd también preguntas del grupo socialista labor de grupos de la oposición que han permitido destapar estos hechos y que nos han ido permitiendo conocer datos día a día mes a mes datos nuevos que corroboran aquella preocupación preocupación que dejaba al descubierto que mediante un sistema

el departamento de educación en aquel momento pero no solo este sino que también otros departamentos del gobierno vasco contrataban espacios de publicidad encubierta que bajo la apariencia de contenidos de información y en clara connivencia con esos medios del grupo noticias

la propaganda del gobierno del pnv en una clara estrategia de manipulación que se pagaba a dichos medios para que ofreciesen a la medida y el deseo del gobierno vasco en otras palabras se compraba esa información una clara estafa informativa a nuestro juicio

con el ánimo de influir en la opinión pública no han tenido reparo en utilizar de manera repetida por lo que hemos conocido

cuatro departamentos del gobierno vasco vulnerando para ello todos los principios éticos que deben regir la política de comunicación de cualquier administración pública y lo que aún es más grave vulnerando la propia legalidad vulnerando la ley vasca de publicidad y comunicación

por ejemplo en lo que se refiere en concreto a su artículo cinco que establece expresamente en su apartado de prohibiciones dice no se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad o de comunicación

obstaculicen o perturben las políticas públicas o cualquier actuación legítimamente realizada por otro poder público en el ejercicio de sus competencias porque les recuerdo

sobre estas prácticas porque se pagaba con dinero público publicidad disfrazada de información para deslegitimar y generar una opinión contraria

una vez que había sido ya aprobada por el gobierno de españa incluso contratando espacios una vez que ya

aprobada por las cortes generales pero también se vulneraba otro apartado de ese artículo otro apartado que queda vulnerado

por parte de los diferentes departamentos porque dice textualmente

no se podrán difundir campañas institucionales de publicidad

y que no incluyan la mención expresa de la administración o entidad promotora o contratante este artículo lo han incumplido ya demasiadas veces y ello supone un enorme fraude político que hoy volvemos a denunciar

denunciando un hecho a nuestro juicio de extrema gravedad absolutamente irregular que curiosamente siempre ha contado con el mismo

el mismo grupo de comunicación siempre el mismo grupo de comunicación ha sido el cómplice necesario para estas prácticas el grupo noticias

y onda vasca ellos ese grupo

han sido beneficiarios económicamente de esta práctica

inadecuado y en nuestra opinión fraudulento del dinero público y de un uso perverso de la información porque

desde esos medios de comunicación se estaban engañando a sus lectores a sus oyentes

el gobierno vasco demuestra con esto un desprecio absoluto al papel que deben jugar los medios de comunicación en una democracia

nos pareció claramente insuficiente peor nos pareció contradictoria inconsistente pero

la consejera aquel día casi entonó el mea culpa dijo aquello de esto no volverá a ocurrir incluso en comisión

era una práctica de su gusto y que iba a poner los medios necesarios para recuperar el dinero porque en sede parlamentaria

de no haber cumplido con el contrato digamos propuesto al gobierno en aquel momento nos quedamos sorprendidos

requiere exigencia de la devolución del dinero bien ante el requerimiento de otros grupos

en aquellas mismas fechas escuchamos también a los consejeros erkoreka

sin éxito de confundir desviar tergiversar y en todos los casos esquivar el problema sin asumir ningún tipo de responsabilidad

en aquel momento de rectificación al revés todo lo contrario mantuvieron un discurso justificador

en aquel momento todavía en el mes de junio se mantenía por parte de los representantes del gobierno un discurso que justificaba ese modus operandi bien pero a medida fuimos conociendo nuevos datos se engordaba el escándalo y afectaba además ya a cuatro departamentos educación cultura y política lingüística empleo y políticas sociales salud y presidencia y todos los grupos de la oposición forzaron finalmente al lehendakari a tener que

permanente en el mes de julio y resulta que el empeño del pnv se centró en ese momento en separar y distinguir entre patrocinios y campañas de publicidad

diferentes para minimizar su responsabilidad curioso curiosos los patrocinios en los que el patrocinador prefiere no aparecer

qué curioso esa manera de patrocinar en la que se trata de que no figure el patrocinador en el evento o en la información patrocinada

el patrocinio es una forma de publicidad no es algo diferente a ella es una forma de publicidad que utilizan las empresas también las administraciones no es algo diferente a la publicidad es lo mimos es una forma de la publicidad

publicidad ilícita si vamos a donde nos definen qué se entiende por publicidad ilícita bueno pues nos dicen que hay dos tipos una un tipo

aquella publicidad que atenta contra la dignidad de las personas y señala además muchas variantes y dos el segundo tipo

tiene dos acepciones la segunda es la publicidad engañosa

aparecer de diferentes maneras la primera es la que se tiene como publicidad encubierta que se da esto no lo digo yo es lo que dicen que se da cuando el destinatario no es consciente de que dicha manifestación constituye una actividad publicitaria

difundido por un tercero imparcial ajeno al anunciante se produce un engaño

porque al no reconocer la publicidad lo que es publicidad otorgan mayor credibilidad a dichos contenidos nos encontramos hablando señorías

que define mejor dicho que deja al descubierto cuál es el concepto que el lehendakari y el pnv su gobierno tienen de lo que significa el derecho de una sociedad a una información veraz de la publicidad de la equidad del papel que tienen que jugar

nos encontramos denunciando una chapuza administrativa una conducta que nos parece impropia

hace un uso del poder un abuso del poder que hoy queremos volver a reprochar y queremos volver a reprochar esta actitud y esta manera de actuar por parte del gobierno vasco por parte del gobierno del pnv tratando de buscar

que pueda recoger la posición de una mayoría de esta cámara y por eso hemos querido presentar hoy y creo que se ha repartido ya una enmienda de transacción con el grupo

que trata de recoger una posición amplia que pueda ser respaldada en esta cámara

a plantear una serie de cuestiones seis en concreto la primera recordar y es triste que tengamos que volver a hacerlo recordar al gobierno vasco que el principio básico y fundamental que debe

y objetiva ordenada y orientada a la difusión de los servicios que presta y las actividades que desarrollan y no a otras cosas

del artículo cinco punto tres de la ley seis barra dos mil diez de publicidad y comunicación institucional que establece expresamente como antes decíamos que la publicidad institucional no debe conducir a errores

tres rechazar la realización de patrocinios y publicidad encubiertos

e instar al gobierno vasco a que se abstenga en el futuro de realizar

que no se identifique claramente como tal y que no incluya la mención expresa de la administración o entidad promotora o contratante volvemos a denunciar la vulneración del código ético y de conducta sobre la honestidad en el ejercicio del cargo público cuatro requerir al gobierno vasco a adoptar cuantas medidas administrativas sean necesarias a fin de lograr

indebidamente administradas que devuelvan el dinero aquellos que cobraron cantidades de manera irregular cinco censurar la utilización de fondos públicos para

a determinados medios de comunicación afines lo que representa una financiación ilegal de los mismos que además de fomentar una competencia desleal en el sector

exijamos la devolución de esas cantidades y por último instar al gobierno vasco a limitar al máximo la contratación de espacios públicos en medios de comunicación que no se encuadren en las campañas generales que deben ajustarse en todo caso

regla de oro en la práctica en la comunicación de una administración pública a los principios de publicidad concurrencia transparencia igualdad
y no discriminación nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna

gracias presidenta hemos firmado y vamos a votar una transaccional donde se incluyen las

planteadas por upyd en la enmienda de totalidad que presentamos reivindicaciones que fueron ya defendidas en otros debates previos

ya aprobadas en su momento pero en todo caso y quizás de todos esos puntos cabría destacar en general todos ellos pero quizás cabría destacar el punto número cuatro con el que exigimos al gobierno vasco

administrativas sean necesarias a fin de lograr la reversión al erario público de aquellas cantidades indebidamente administradas y pagadas al grupo nosotros esperamos exigimos en todo caso al gobierno que efectivamente recupere ese dinero que corresponde a la ciudadanía vasca y que voluntariamente el gobierno vasco a un determinado medio de comunicación ya discutimos sobre la cuestión cuando se conocían cinco casos de ilegal que implicaban a cuatro departamentos del gobierno vasco lo cierto es que hoy conocemos siete nuevos casos destapados por upyd en total

a todos los departamentos del gobierno vasco y donde se incluyen entrevistas a miembros del gobierno vasco un absoluto escándalo el gobierno vasco paga para que los medios entrevisten a sus miembros siete nuevos casos por lo tanto destapados por upyd en las últimas semanas y voy a explicar cuáles son uno

de un autor sin ninguna referencia a que es publicidad pagada por el gobierno vasco o un espacio patrocinado por el departamento de educación política lingüística y cultura

euros publicado el siete de diciembre de dos mil trece a finales de año este también es un dato relevante que dice mucho y que explican

para que cuadren determinadas cuentas dos reportajes del departamento de empleo y políticas sociales sobre servicios sociales veinticinco mil quinientos euros más iva diario de noticias de álava ocho mil euros más iva diario de noticias de gipuzkoa zortzi milaeuros más iva no nos envían todas las copias pero

entrevistas pagadas en deia no se hace ninguna referencia a que es publicidad en el diario de noticias de gipuzkoa se sitúa en el encabezado

se dice publicidad sin decir quién la paga

tres reportajes del departamento de educación sobre ciencia e investigación en deia ocho mil doscientos veintiocho euros diario de noticias de álava casi ocho mil euros y diario de noticias de gipuzkoa casi

con varias irregularidades tampoco nos envían todas las copias pero hay varias entrevistas pagadas entre septiembre y diciembre de dos mil trece

de año cuatro reportajes del departamento de seguridad sobre emergencias en deia diario de noticias de álava y diario de noticias de gipuzkoa por importe

euros ninguna referencia a que es publicidad pagada quince de diciembre de dos mil trece otra vez de año cinco reportajes de doble página del departamento de medio ambiente piensa en verde en los tres medios del grupo noticias

sin ninguna referencia a que es publicidad pagada veinticuatro de noviembre de dos mil trece otra vez a finales de año seis reportaje de doble página del departamento de administración pública y justicia el contrato es con los tres medios del grupo noticias por doce mil euros pero solo se nos ha adjuntado las copias ninguna referencia a que es publicidad pagada aparece también se incluye la entrevista pagada a un viceconsejero trece de octubre de dos mil trece

de año y siete programas de la spri en onda vasca

euros en los audios adjuntados se comprueba que no hay ninguna referencia a que sean

por el gobierno vasco estos doce casos suponen ya la cifra de

que han servido para financiar ilegalmente a un grupo afín al partido nacionalista vasco upyd por lo tanto con estas actuaciones

de información documentada con este trabajo parlamentario en definitiva ha destapado las artimañas del partido nacionalista vasco las corruptelas del partido nacionalista vasco y en definitiva las malas artes del partido nacionalista vasco hubo además consejeros que mintieron

para tapar sus vergüenzas y esto también vamos a traerlo próximamente a pleno para que se repruebe en concreto a un consejero que deliberadamente mintió en sede parlamentaria para tapar estas corruptelas estas malas artes del gobierno y del partido nacionalista vasco los cinco primero casos están ya en los juzgados

días llevaremos a la justicia los últimos siete casos descubiertos por upyd los posibles delitos son extraordinariamente graves estamos hablando de fraude a las administraciones públicas de prevaricación

de fondos públicos además es posible que haya más casos el gobierno vasco que habla de transparencia no aporta toda la documentación

de información documentada trece casos que afectan todos ellos a la emisora onda vasca también del grupo noticias el gobierno no nos ha enviado

o publicitarios pagados por el gobierno vasco el importe de estos contratos sobre los que no podemos saber si se cumplió la ley

euros en estos casos la ocultación de información implicados todos los departamentos del gobierno vasco excepto el de seguridad en fin y en conclusión estamos hablando de hechos extraordinariamente graves que merecen la censura de este parlamento
en nuestra opinión en breve lo iremos viendo tendrán consecuencias penales para miembros del gobierno vasco gracias eskerrik asko

señorías egun on guztioi la prevalencia de intereses privados y o particulares sobre el interés general en el ejercicio de lo público está hoy tipificada como corrupción en todos los códigos de conducta vigentes en el mundo

y distintos grados pero detraer recursos del erario público para favorecer una causa particular en este caso la cuenta de resultados de unos medios de comunicación afines ideológicamente al gobierno es una mala práctica

y por lo tanto rechazable y que esto ha sido así suficiente evidencia documental la propia trascripción de la comisión de educación celebrada el dieciocho de junio de dos mil catorce

no necesitamos pagar para decir cuál es la posición del gobierno y tiene razón la señora uriarte no necesita pagar para decir cuál es la posición del gobierno

pero sin embargo paga paga para qué para quiénes

o cuando afirma la señora uriarte también nosotros no decidimos nada ellos decidieron todo ellos señorías es el grupo de noticias

exactamente la verificación de que el gobierno paga impunemente y sin control del resultado a individuos grupos de confianza que proponiéndole primero una determinada inserción publicitaria convierte luego en una mesa supuestamente técnica de reflexión con juristas que no fue así y finalmente

en una radio señorías esto es francamente preocupante

tremendamente serio y mejoraría el gobierno vasco en calificarlo como tal

tratar de salirse del asunto con apelaciones cínicas tales como siempre se hace así pues si vieran ustedes otros casos esto lejos de disminuir la preocupación que nosotros como responsables políticos hemos de tener

lo que hace es aumentarla aumentarla de manera grave

ni de publicidad institucional legítima que tiene que comunicar a la ciudadanía a los administrados cuestiones de interés general esa es la publicidad institucional no estamos hablando de eso eso no ha existido ninguna comunicación de interés general

ni tampoco estamos hablando de patrocinio que patrocinio es aquel que como se ha dicho aquí oculta la identidad del órgano financiador

y que además habla de causas que son bombo mutuo bombos autosatisfactorios de aquel que anuncia de aquel que lo dice no estamos hablando de eso señorías no había ninguna necesidad de hacerlo señorías

ante casos de mera propaganda institucional propaganda clandestina institucional estamos hablando de un gobierno que unas veces paga y otras no a grupos de confianza a los que ni siquiera controla

y que canta las alabanzas de su gestión y esto señorías es un engaño a la ciudadanía es una perversión clara de la relación entre poder político y medios de comunicación en una

porque abusa del elogio del órgano pagador para castigar a la oposición sistemáticamente cambia las reglas de juego democrático es una vulneración además de la ley de publicidad y comunicación institucional porque va en contra de lo que esta ley prevé

nunca puede cargar contra las políticas de otro poder político porque además tiene que quedar claro quién hace esa publicidad por lo tanto

la vida pública no ocurre en el vacío y este es un comportamiento profundamente inapropiado este incidente implica

que hacer en términos de internalizar los principios exigibles de la vida política los principios que realmente tienen que ser

de imparcialidad servicio responsabilidad y transparencia por eso señorías empezar a curar empezar a reparar el tejido enfermo

en su verdadera dimensión una cuestión que no se ha producido con la excepción de la señora uriarte en comisión de educación segundo calificación como asunto grave tercero no volverá a repetir cuarto la devolución y este es un asunto en el que vamos a hacer causa grave la devolución apenas hace

el viernes pasado en ámbito parlamentario tuvimos la ocasión de oírle al señor lehendakari afirmar que si bien era legítimo

indebidamente pagadas en este asunto por parte de la diputación permanente en julio

para conseguir la recuperación de dicha cantidad dineraria opinamos exactamente lo contrario

en contra de esa opinión él afirmaba que el contrato había sido cumplido en todas sus partes no ha sido cumplido en todas sus partes

cómo va a ser cumplido en todas sus partes cuando primero se propone una inserción publicitaria que se convierte en una mesa técnica señorías en la que nadie opinaba contrario para más tarde ser cambiada por las entrevistas sin control del gobierno

en los medios de comunicación afines como para dejarles hacer por tanto no ha habido cumplimiento del contrato

señorías aquí se ha vulnerado de manera flagrante la ley de publicidad y comunicación institucional y en la vulneración de una ley cualquier contrato tiene vicios de procedimiento

por tanto señorías y por concluir nosotros el grupo socialista al que represento hace causa grave de la devolución de la recuperación de las cantidades dinerarias que inadecuadamente inapropiadamente salieron del erario público y qué cantidades señorías luego no hay dinero suficiente ni para la educación ni para las becas de excelencia

por tanto sostenemos que el dinero es recuperable y sostenemos también que el gobierno ha de retratarse en esta cuestión tiene que buscar

oportunas para recuperar las cantidades dinerarias y devolverlas al erario público del que nunca debieron salir porque han salido

por tanto señorías si esto no es ilegal qué otra cosa será y es muy importante que este gobierno lo califique como tal lo califique como grave y empiece a sanar el tejido haciendo sus deberes para nada le va a servir

sabemos perfectamente de qué estamos hablando y tenemos el firme propósito de corregirlo por eso vamos a seguir muy atentamente este asunto y por esohemos transado una proposición no de ley que reitera en términos generales la que fue aprobada en la diputación permanente el pasado mes de julio nada más y muchas gracias

indarrean daude praktikan daude eta hori ez zaigu batere zuzena iruditzen luego por lo tanto estamos ante un debate nada

es repetitivo reiterativo y no aporta nada nuevo y por lo tanto desde nuestro punto de vista carece de

es comprobar cómo algunos de manera torticera tratan de negar la realidad y tratan de negar se han adoptado toda una serie de medidas toda una serie de compromisos tal y como el lehendakari manifestó el pasado siete de julio en esta misma cámara

en consecuencia por mi parte no me queda más que reiterar algunas ideas principios y compromisos ya sobradamente expresados y sobre todo lo que es más importante

ya puestos en práctica por el gobierno vasco en primer lugar existe una inequívoca voluntad y práctica de la transparencia en este tema

el compromiso político del gobierno vasco y prueba de ello son los informes remitidos a esta cámara se han remitido o no hori praktika da edo zer da

desde el pasado siete de julio ningún patrocinio desarrollado por el gobierno vasco

al departamento u organismo de la administración general de la comunidad autónoma vasca promotor o contratante de dicha actuación hori zuzenduta dago

inguruan txosten bat y como ya afirmó el lehendakari y cito literalmente lo que el dictamen de esa comisión ética señaló la comisión no aprecia motivos para considerar que en el ámbito de la publicidad y la comunicación institucional

de la regla ética básica que impone a los cargos públicos la observación

bermatzeko neurriak hartu dira antes de terminar quisiera abordar alguna serie de afirmaciones que se han realizado en el transcurso de las intervenciones de los diferentes portavoces y que en mi opinión son incorrectas más allá creo que tergiversan conceptos los confunden y nos sumen en una auténtica confusión

es muy importante recordar que todos los contratos suscritos por el gobierno con los medios de comunicación

íntegra efectivamente han seguido los procedimientos administrativos y han contado con los consiguientes controles presupuestarios y de legalidad internos estamos convencidos de que se ha cumplido

la actuación y el procedimiento seguido por el gobierno vasco en el dos mil trece es el mismo que el seguido en los años dos mil once

el mismo los patrocinios realizados en el dos mil once y dos mil doce no tuvieron la consideración de campañas institucionales de publicidad

sí lo tengan me puede explicar alguien por qué se habla del grupo noticias evidentemente bildu no quiere entrar en ese debate porque bastante le castiga en gipuzkoa y en donosti bastante pero se ha acusado al gobierno de no ser equitativo

los datos presentados en las memorias por favor si lo leen rebaten completamente esta afirmación el gasto en el grupo noticias en el año dos mil trece

del total de las campañas institucionales de publicidad y los patrocinios

el trece coma nueve por ciento por tanto se trata de un gasto ajustado y proporcionado para un grupo de comunicación que cuenta con tres periódicos

un grupo que alcanza una audiencia del diecinueve coma veinticinco por ciento hagan el razonamiento si el grupo noticias ha recibido el trece coma nueve

hay grupos porque efectivamente tienen más audiencia que han recibido mucho más por qué porque esta actuación como la otra es ajustada y proporcionada los patrocinios no son publicidad los patrocinios no son publicidad

señor oyarzabal usted hace una interpretación y otros portavoces que es torticera que se confunde que no responde a lo que dice la ley en la ley

institucionales de publicidad y se habla de campañas

institucionales de comunicación

los patrocinios no son iniciativas que parten del gobierno parten de los medios de comunicación y por lo tanto el gobierno no elabora esos patrocinios y el contenido de esos patrocinios eso explica

es muy importante resaltar que el gobierno ha recibido hasta el siete de julio de este año peticiones de patrocinio por parte de catorce medios de comunicación catorce no solo uno catorce el patrocinio no es publicidad

clarísima en la ley del año dos mil diez porque sino cómo es comprensible que no se cite a la figura del patrocinio

y que es tan usual el patrocinio se acerca bastante a lo que puede ser el mecenazgo

el contenido de ese evento o de ese hecho patrocinado señorías sinceramente creo que es importante tener un compromiso político

cada cual en su nivel de responsabilidad con la transparencia y con la honestidad a la hora de tratar estos asuntos sin caer en exabruptos en exageraciones

a veces uno se lo imagina creemos que este gobierno lo está demostrando está demostrando su compromiso con la transparencia y lo está haciendo lo está haciendo en la práctica
profundizando en controles necesarios como acabo de explicar amaitzen joan uribe etxebarria jauna para que la ética democrática sea un principio rector de la praxis política en euskadi

a todos y cuando digo a todos digo a todos eskerrik asko uribe etxebarria jauna erantzunen txandara pasatuz oyarzabal jauna zurea da hitza

es que nos está contando siempre la misma historia como si nosotros nos tuviesemos que tragar la versión que da el pnv

es que oiga que el patrocinio ya sabemos lo que es es que además es que no tenemos que aquí yo no vengo de experto como usted yo vengo a

no lo digo yo se lo traigo escrito porque vamos de quien define es es el convenio entre una persona jurídica

la marca o el producto que desea promover la empresa patrocinadora

como las informaciones pagadas supone un claro exponente de la publicidad engañosa y fraudulenta

que no lo digo yo es que vamos a ver esto no es bueno esto ya está inventado es que hay empresas

en los propios medios de comunicación es que hay empresas grupos económicos grupos farmacéuticos que se dedican a patrocinar informes

informes para que se den unas conclusiones determinadas y luego además se dedican a patrocinar de manera oculta a medios de comunicación para que trasladen las conclusiones de esos informes de manera interesada eso ya claro que se conoce esto ya sabemos cómo funciona hay quien a través de los patrocinios ocultos

trata de difundir informaciones interesadas esto es de lo que estamos hablando

informes encargados y pagados para que se den determinadas

lo que estamos denunciando aquí no son patrocinios

para denominar como patrocinios algo que no lo es no es patrocinio el pagar informaciones

sin que los oyentes sin que los lectores conozcan que se trata de publicidad pagada o patrocinada

y sino por qué resulta tan contradictoria

claro que realizan patrocinios realizan patrocinios de eventos deportivos de eventos culturales

que no tiene nada que ver con lo que estamos denunciando aquí los patrocinios como tales no se oculta el patrocinador el gobierno aparece en los patrocinios que contrata de manera abierta y por supuesto por qué entonces sino todo lo que patrocina el gobierno todo los patrocinios del gobierno fuera de lo que son campañas de publicidad como usted dice

el gobierno se publicita en todo tipo de eventos y las noticias patrocinadas

en los medios de comunicación de otros grupos por ejemplo usted ha hablarlo de no es que aquí estos se han llevado solo no sé qué tanto por ciento

en el grupo vocento lo que usted llama patrocinios va con el sello del gobierno vasco por qué casualmente estos hechos que denunciamos

por qué por qué el gobierno vasco y los departamentos actúan de una manera cuando contratan con unos medios de comunicación

cuando contratan con el grupo noticias oiga es que de eso estamos hablando es que ustedes porque no saben cómo salir de esta porque como les dijeron

ahora dicen que todo es patrocinio y no es patrocinio usted sabe perfectamente que no es patrocinio y si lo fuera

cuando se actúa solo a requerimiento de los grupos de la oposición y a remolque de las peticiones de información de los grupos solo faltaba que el gobierno negase información

la obligación de facilitar se escudan en un informe de la comisión ética que no se sostiene

porque el gobierno y los propios departamentos vienen actuando de otra manera en estos mismos términos cuando se trata de patrocinios aquí no se trata de patrocinios se trata

ustedes a esos contratos que además han sido incumplidos porque se planteaba una cosa e hicieron otra

estamos hablando de uso fraudulento del dinero público estamos además denunciando y termino ya señora presidenta

mediante un texto que yo creo que supera el que aprobamos el que aprobó en esta cámara en julio

yo creo que lo refuerza y además es contundente porque ustedes aquí

no se corresponde con lo que manifestó el lehendakari vienen aquí a justificar

lo que hicieron oiga porque si ustedes reconocen que lo que hicieron no lo van a volver a repetir

qué hicieron mal entonces por qué nos viene a justificar que esto es patrocinio porque no lo es

no tiene ningún interés cómo que no tiene ningún interés hechos de esta gravedad creo que usted tiene que tener la valentía de venir aquí y de responder de reconocer los errores de decir exactamente cuáles van a ser las medidas y decir si van a cumplir

no tienen ningún interés que volvamos a reclamar aquí que cumplan el mandato de julio oiga creo que tiene suficiente interés porque se trata de

gracias presidenta señor uribe usted ha protagonizado una de las intervenciones

y penosas que se han hecho en este parlamento al menos durante los últimos cinco años hay que tener rostro como para poder acumular

y tantas patrañas en una intervención de diez minutos en fin usted dice que el gobierno ya ha dado las explicaciones que correspondían

todo lo que ha ocurrido en relación a esta cuestión y acusa a los miembros de la oposición de negar la realidad de confundir y de llevar acabo interpretaciones

señor uribe etxebarria reconozcan cuanto antes lo que ustedes han hecho tengan humildad

reconozcan puesto que efectivamente les hemos pillado en una ilegalidad evidente ahora lo que hace el gobierno es en fin comprometerse a llevar a cabo determinadas actuaciones de cara al futuro y lo que ustedes han hecho en el pasado qué de eso es de lo que estamos hablando de lo que ustedes han hecho en el pasado del dinero que se ha robado

para trasladar ese dinero a unos determinados medios de comunicación amigos del partido nacionalista vasco esto es lo que ha ocurrido en el pasado veremos si ocurre en el futuro pero en el pasado ha ocurrido esto

cuando lo que han hecho ha sido responder a los requerimientos de los grupos parlamentarios y ni siquiera han aportado toda la documentación hay audios

al parecer han desaparecido y no han llegado a los diferentes grupos parlamentarios cuando lo pidió upyd no han llegado esos audios están destruyendo ustedes pruebas dónde están esos audios quién me comparaba la semana pasada

por aquello de la propaganda en fin por denunciar el derroche de dinero público producido en los fiascos de epsilon y de hiriko quién me comparaba con goebbles creo que está aquí presenta

con el dinero de los ciudadanos ustedes el gobierno vasco y el partido nacionalista vasco por lo tanto el gobierno vasco del partido nacionalista vasco fondos públicos es decir dinero de los ciudadanos para financiar a un medio de comunicación afín al partido nacionalista vasco y al gobierno vasco ilegalmente vulnerando la ley esto es efectivamente lo que ha ocurrido no hable de patrocinios

o un congreso no estamos hablando de patrocinios estamos hablando de ilegalidades del robo de dinero público de los ciudadanos para entregárselo

amigos del partido nacionalista vasco y qué es lo que puede hacer ahora el gobierno vasco y el partido nacionalista vasco yo creo que en primer lugar actuar con humildad

no sabe hacer señor uribe no lo sabe hacer no tiene efectivamente demasiadas salidas lo que podría hacer y lo que debería hacer el gobierno vasco efectivamente es pedir públicamente perdón por lo que se ha hecho reconocer los hechos admitir que han sido descubiertos prometer que no volverán hacerlo

el dinero que nos han robado esto es lo que ustedes tienen que hacer y lo que les pide este parlamento que recuperen ese dinero que dejen de manipular que dejen de engañar

los hechos y por cierto también lo que tiene que hacer el gobierno vasco colaborar con la justicia colaborar con la justicia creo que ya la justicia está actuando efectivamente y está pidiendo datos y documentos al gobierno vasco el gobierno vasco tiene que hacer todo esto y además colaborar

ustedes efectivamente lo tienen mal porque les hemos descubierto es un hecho ha habido incumplimiento fragrante de la ley por lo tanto no les queda otra que reconocerlo

tengan ustedes humildad y desde luego lo que tiene que hacer el gobierno es recuperar el dinero recuperar ese dinero es un dinero de los ciudadanos y admitir y asumir cuanto antes

que puedan surgir de estos asuntos es un asunto extraordinariamente grave cuanto antes señor uribe corrija el camino emprendido durante los últimos meses cuando ha tenido que intervenir reconozca que se ha equivocado hagan todo lo posible para recuperar ese dinero y para asumir cuanto antes

y las penales que estamos seguro que van a llegar en breve eskerrik asko maneiro jauna

señor uribe etxeberria qué mal papel

de hoy qué mal papel le han hecho hacer de materia inerte literalmente

de verdad cómo se atreve usted a empezar a definir patrocino

oiga un gobierno al que se le hizo por ustedes una oposición de tierra quemada

no señor uribe etxebarria no señor uribe etxebarria aquí estamos ante un caso de propaganda clandestina del gobierno y con mucho dinero con muchísimo dinero cuando no hay dinero para otras cosas

fuera solamente para el grupo de noticias fuera de todo lo que era la propaganda general la publicidad general

como me dice usted ahora que si es patrocinio deja de ser lo propio el requisito esencial del patrocinio es que el patrocinador por interés de patrocinador esté presente no esté oculto

cuando la propia consejera de educación en respuesta a este parlamento respuesta escrita habla de publicidad justificada

eso está escrito es decir es verificable mire usted ha tenido usted una mala papeleta ha tenido usted una mala mañana ni siquiera una mala tarde una malísima mañana

tiene muchísimo interés y va a seguir teniendo interés en tanto el gobierno no adquiera los compromisos de empezar a reparar el daño causado y a devolver usted dice mire usted pero si ya el señor lehendakari hizo aquí el viernes una

es que esto no tenía importancia que era simplemente una cadena de errores algunos errores es a lo máximo que han llegado ustedes ni a tipificarlo como grave ni a tipificarlo como lo que es realmente ni publicidad institucional ni patrocinio propaganda

del gobierno para cantar sus alabanzas para tener un juglar de la reina doméstico y domesticado al que ni siquiera sigue y que sencillamente confió porque son amigos que hagan como buenamente quieran

aquí hay un incumplimiento clarísimo y fragrante de la ley y ahí un incumplimiento clarísimo y fragrante

del contrato reconocido por la propias señora uriarte que hicieron porque hicieron otra cosa distinta a la que a ellas le dijeron por lo tanto lo hay

que la comisión de código ético del gobierno se reunió y que no hallaron un incumplimiento que había dicho el lehendakari no hallaron un incumplimiento consciente

vamos a ver si es consciente o inconsciente eso tendrá que dirimirse pero lo que no hallaron lo que dijeron es que no había un incumplimiento

el adjetivo calificativo enuncia la verdad del sustantivo

o inconsciente aquí estamos para dirimirlo y nosotros pensamos que es consciente y otros ustedes querrán decir que es inconsciente me tiene que decir aquí si efectivamente este gobierno esta dispuesto a calificar esta conducta como grave a no volverla a repetir para no reincidir

que indebidamente salieron del erario público y que pertenecen a todos los vascos y a todas las vascas que las necesitan para las políticas de bienestar social porque en este momento señorías hay mucho sufrimiento en la calle y no podemos estar gastando estas cantidades ni en publicidad
ni mucho menos en propaganda clandestina nada mas y muchas gracias eskerrik asko celaá andrea

ampliamente comprobado y creo que no solo nosotros sino otros grupos de esta cámara que su cultura política la basa en la mentira los prejuicios las manipulaciones

no le voy a añadir nada más en ese sentido yo lo que he dicho es en primer lugar que el gobierno vasco

adquirió toda una serie de compromisos que los ha puesto en práctica es curioso escuchar cómo se nos pide que hagamos cosas que ya se están haciendo lo cual me lleva a pensar que lógicamente no se escucha

lo que se dice y hay pruebas de ello los informes cuatrimestrales que se envían a esta cámara eso es algo objetivo antes era uno por cierto que comenzó este gobierno uno anual ahora son

por lo tanto eso es algo absolutamente objetivable se ha dicho y se ha repetido que ahí hubo un error que no era una cuestión del propio gobierno vasco que lógicamente cuando patrocina

evento no aparezca su nombre su identidad eso se dijo y se dijo desde el siete de julio o incluso antes

sí lo hemos dicho bien a partir de ahí el dinero también se ha dicho

que se ha pedido al mismo tiempo un informe jurídico para ver qué posibilidades hay eso se ha dicho y sin embargo se obvia se obvia

y se han dado datos en relación al grupo de comunicación que ustedes dicen que nosotros hemos favorecido se dan datos

en términos de publicidad y patrocinios que es el trece coma nueve cuando tiene un peso en la audiencia del diecinueve

entonces lógicamente comprenderán mi contrariedad

y usted que tanto aprecia la universidad por lo menos tenga un poquito de respeto en relación a este parlamentario un poquito de respeto porque desde luego

y le sobra mucha soberbia y mucha demagogia y le falta responsabilidad en esos planteamientos y podemos hablar del control de los medios de comunicación y podemos hablar de la época del señor zapatero

y podemos hablar de otros y podemos hablar de telefónica y eso de pagar a en fin no me quiero meter señor oyarzabal no me quiero meter incluso aunque sea algo

actual insisto en que esto era un patrocinio y por lo tanto no publicidad la ley de publicidad habla de campañas institucionales de publicidad y campañas institucionales de comunicación incluso

si nos acercáramos o acercáramos el concepto del patrocinio a la campaña institucional de comunicación incluso ahí no existiría la obligación de identificar lo dice la propia ley

esto no es publicidad se trata de patrocinios se cometió un error que ya se ha resuelto y creo que tenemos que mirar adelante con los compromisos insisto que ha adoptado este gobierno que son el de la recuperación del dinero efectivamente el juez lo determina así rechazando como rechazamos que haya habido un trato de favor a un grupo de comunicación y los datos también están ahí

muchas gracias señora presidenta señorías la señora consejera

este protocolo en los medios de comunicación protocolo de colaboración entre la administración general de la comunidad autónoma de euskadi

para el buen funcionamiento y dinamización de los puertos vascos pues sobre este protocolo hoy queremos hablar los

en dicho protocolo en la exposición de motivos decía que euskadi está ubicada en un punto estratégico europeo un territorio eslabón clave del eje atlántico europeo

muy completa que permite el acceso a cualquier punto de europa por la red terrestre red ferroviaria

señorías este párrafo es el único que los socialistas podemos estar de acuerdo

ha dejado salvado porque el resto lo ha considerado

pero es que el gobierno sigue diciendo lo siguiente leamos pues que el aprovechamiento pleno de estas infraestructuras convirtiéndolas en la gran puerta marítima de europa exige el reforzamiento del posicionamiento y liderazgo de los puertos de bilbao y pasaia una muestra más de la demagogia de este gobierno

el liderazgo del puerto de bilbao el puerto de pasaia cuando no hace mucho tiempo

ha dejado en un cajón un proyecto que sí haría del puerto de pasaia ser líder que es el puerto exterior

y en vez de trabajar en favor de ese proyecto lo que hacen es este protocolo del que vamos a debatir

a hablar que como ya le he adelantado la autoridad vasca de la competencia dice que vulnera

pero vamos a ir desgranando el protocolo de uno en uno siete cláusulas la primera objeto del protocolo segunda objetivos tercero compromiso cuarto seguimiento y control quinto adhesión sexto vigencia del protocolo y séptimo naturaleza

uno objeto del protocolo en cuanto a esta cláusula la autoridad vasca de la competencia dice en primer lugar que las tres entidades firmantes es decir puerto bilbao puerto pasaia y puerto bermeo no están sometidas a la misma regulación y no existen

además que los puertos son empresas competidoras entre sí por ello las acciones de colaboración y cooperación entre ellos deberán respetar

cualquier técnica cualquier práctica que elimine o limite la competencia ínter portuaria lo que pretendía hacer este gobierno

en el sentido de que dos puertos en cuestión en colaboración con la administración general de la comunidad autónoma vasca se disponen a llevar un pacto de no competencia entre ellos por lo que dicha cláusula no resultaría admisible desde el punto de vista de defensa a la competencia por lo tanto señorías para ser didáctico vamos a ir tachando

dice que no están de acuerdo a la ley vayamos al segundo la segunda cláusula son los objetivos qué dice de esta cláusula la autoridad vasca de la competencia pues le leo apartados c d

a estrategias conjuntas de optimización de oportunidades presentes o futuras a explotación de sinergias entre los puertos

a determinación de las tasas y bonificaciones aplicables a los tráficos

a gestión colaborativa y coordinada que contribuya a un sistema portuario cada vez más eficiente y sostenible a imagen exterior común y a desarrollar una política comercial conjunta respecto de ciertos tráficos podrían ser considerados al menos

al ámbito económico comercial de estos entes como acuerdos entre competidores para impedir o restringir la competencia el artículo uno de la ley quince barra dos mil siete de defensa de la competencia prohíbe todo

práctica concertada o conscientemente paralela que tenga por objeto produzca o pueda producir el efecto de impedir restringir o falsear la competencia es decir lo que hace esta cláusula dos vamos a ir tachándola

compromisos esta cláusula reincide en lo manifestado respecto a las dos cláusulas anteriores desde una perspectiva de la actividad económica comercial

incompatibles con la obligación de competir entre los operadores económicos no se puede competir de forma leal si de forma simultanea se debe colaborar

por lo tanto la autoridad vasca de la competencia también dice que este artículo vulnera la ley otro menos

es el mecanismo de colaboración el consejo vasco de la competencia dice que en virtud de esta cláusula quinta las partes se comprometen a elaborar un plan de colaboración respecto a aspectos como la política comercial de los puertos sus tráficos los servicios portuarios

los cuales no pueden ser en modo alguno objeto de colaboración entre competidores sino fruto de una decisión de cada empresa sin condiciones devenidas de la obligación de colaboración por lo tanto este artículo cuatro bis o cinco señorías también

en definitiva señorías la autoridad vasca de la competencia dice que cuatro

este protocolo vulneran la ley no me quiero ir sin ir a esos tres que se salvan

cláusula cuarta seguimiento y control mediante esta cláusula el gobierno pretendía crear un organismo una comisión de seguimiento

de los objetivos de la cláusula dos que les recuerdo señorías que la hemos tenido que tachar

por lo tanto para qué queremos una comisión de seguimiento de algo que no podemos seguir por lo tanto tendremos que tacharla también

del protocolo en esta se dice que entrará en vigor el día de su firma y que estará en práctica hasta que se denuncie pero señorías qué va a entrar en vigor si no hay contenido ninguno por lo tanto creo que también deberíamos de dejarlo fuera y por último la cláusula séptima naturaleza que dice así

vinculadas legales ni financieras entre los participantes señorías no crea

ni financieras ni ningún tipo de obligación porque esto ha quedado en aguas de borrajas porque no es

por eso como he mostrado en mi intervención el consejo vasco de la competencia dice claramente que este protocolo de colaboración entre la administración general de la comunidad autónoma de euskadi y las autoridades portuarias de pasaia bilbao y el puerto de bermeo contiene

con mayor o menos intensidad en todo lo que afecta a la labor comercial económica de los puertos y añade que el protocolo de colaboración no puede ampararse en la exención de la aplicación de la prohibición del apartado

quince barra dos mil siete tampoco puede considerarse que la totalidad del acuerdo esté exento de la prohibición de atención de la aplicación del reglamento mil doscientos dieciocho barra dos mil diez de la comisión

relativa a la aplicación del artículo ciento uno apartado tres del tratado del funcionamiento de la unión europea

por lo tanto señorías por eso hoy presentamos esta proposición no de ley para que el gobierno vasco archive de una vez por todas este protocolo porque ha quedado en agua de borrajas me gustaría terminar mi intervención yendo al fondo del asunto

gobierno y el partido nacionalista vasco lo que pretendían realmente era dar el primer paso para la unificación de las autoridades portuarias

en madrid cuando era diputado en el congreso y le salió rana

rechazó su proposición ahora parece ser que el partido nacionalista vasco no olvida esa idea y quiere pretenderlo hacer desde euskadi presentando este protocolo pero que lamentablemente la autoridad vasca de la competencia un organismo nuestro

que no puede llevar adelante porque vulnera la ley de defensa de la competencia los puertos de bilbao y de pasaia tienen que ser empresas independientes y competidoras entre sí de una forma

el partido nacionalista vasco se olvide de esta idea de la unificación

y de este protocolo o marco de colaboración entre los distintos puertos porque señorías creo que he dejado bien claro en mi intervención que
vulnera la ley de defensa a la competencia muchísimas gracias eskerrik asko zaballos jauna

eusko jaurlaritzak inste al gobierno vasco a archivar definitivamente el protocolo de colaboración entre la administración general de la comunidad autónoma vasca

la iniciativa original nos parece que el informe del consejo vasco de la competencia es lo suficientemente claro y por lo tanto

egun on buenos días gracias señora presidenta

administración pública y justicia del gobierno vasco solicitó hace un año un informe a la autoridad vasca de la competencia para saber si el borrador de protocolo

de la comunidad autónoma de euskadi las autoridades portuarias de bilbao y pasaia

vulneraba la normativa vigente en materia de defensa de la competencia

en caso afirmativo justificaría la exención de la aplicación de dicha normativa pues bien la autoridad vasca de la competencia emitió un informe en marzo de este año que concluye que sí que sí que vulnera la normativa vigente en materia de defensa de la competencia

y comerciales y no lo hace puntual o excepcionalmente no se soluciona con un retoque del protocolo

el informe concluye que deberían reelaborarse o eliminarse cuatro cláusulas la primera la segunda la tercera y la quinta no las voy a reproducir porque ya nos ha desgranado el portavoz socialista este informe

en este protocolo que abordan al revés son medulares abordan nada menos que el objeto del protocolo los objetivos del protocolo las relaciones

y los mecanismos de colaboración en definitiva que el protocolo que promueve el departamento de medio ambiente y política territorial quedaría más que desvirtuado

de la competencia informe de veinte páginas que fundamenta jurídicamente y se carga de razones

del partido socialista por consiguiente nuestro grupo va a apoyar la proposición no de ley socialistas vascos y es cierto que la autoridad vasca de la competencia es un órgano consultivo cuyos dictámenes no son vinculantes pero leyendo el informe no caben dudas de la conveniencia de archivar el protocolo de colaboración no tiene sentido seguir adelante con el mismo

si a pesar del informe el departamento de medio ambiente y política territorial como nos ha quedado claro

del grupo nacionalista no renuncia a continuar con este protocolo mi grupo no entendería por qué y para qué el gobierno vasco solicita un informe del consejo vasco de la competencia si con su dictamen

y también lo que queda claro es la nula autoridad que le merece este órgano vasco al que el gobierno vasco consulta en materia de defensa de la competencia lo cual también es preocupante porque es lo mismo que decir que le merece su respeto mientras sea un órgano
algo que no ha ocurrido con el informe de este protocolo que el gobierno vasco debiera retirar muchas gracias eskerrik asko ruiz andrea

por apoyar nuestra iniciativa en relación al

porque creo que el informe para nosotros para el partido socialista es bastante claro no le voy a leer esas veinte páginas que todos parece ser que ya hemos leído y que nos hemos informado nosotros creemos que es claro usted dice que donde

podría contravenir nosotros décimos contraviene claro podría contravenir y contraviene si se firma que es lo que estamos pidiendo que no se firme este protocolo si se firma contraviene clarísimamente no podría contravenir en el momento que se firme es cuando la autoridad vasca de la competencia está diciendo

usted dice que es muy abierto yo le leo la última frase de este informe en consecuencia se deberían de eliminar o reelaborar las siguientes cláusulas primera segunda apartados cien

eso es lo que propone la autoridad vasca de la competencia que se eliminen

para que esté de acuerdo a la ley y no la vulnere sino por qué pide que se eliminen si no la vulneran si podría vulnerarla

están exigiendo su eliminación señor urkola

que estemos en contra de la colaboración de este gobierno este gobierno puede colaborar perfectamente ayer me quedó muy claro este gobierno no negocia colabora es lo que me dijo la consejera de medio ambiente y yo creo que aprenderé la lección para la próxima no pedimos que no se colabora con cualquier otra institución o con cualquier otro organismo por supuesto pero dentro de la ley eso es lo que pedimos que se haga dentro de la ley y nuestra proposición no de ley es muy clara lo que se pide es que no se firme este protocolo que la vulnera además ya lo ha dicho la portavoz del partido popular la autoridad vasca de la competencia es un órgano consultivo y vinculante

su informe por donde se lo están pasando directamente

para qué primero lo piden y si no van a hacer caso a la autoridad vasca de la competencia por qué no solicitan que se elimine este órgano

a estos informes supriman esta institución suprímanla

por lo tanto lo que nosotros pedimos es que se respete

la ley y este protocolo si se firma no lo va

reconozcan que no pasa nada reconozcan que se han equivocado con este protocolo la gente somos humanos el partido nacionalista vasco también y cometer un fallo

con el tema de las noticias en los medios pues es un fallo y reconocerlo es de humanos

no está por encima del bien ni del mal ni las instituciones son suyas ni el país vasco

nos tenemos que someter a lo que ustedes quieran muchísimas gracias eskerrik asko

por lo menos no pongan en mi boca cosas que no he dicho y no hablen de la falta de respeto del partido nacionalista a ciertas instituciones

de pasaia y de bilbao con otros del entorno colaboren para tener un sistema portuario vasco fuerte

ahí esté la razón de que ustedes también se unan como se unieron en madrid

una transferencia de puertos para que el país vasco no pueda disponer de un sistema portuario fuerte no vengan con el informe que yo estoy de acuerdo no dice esto es ilegal esto puede crear problemas a la competencia y no dice elimínelo no sea usted tan sativo

la cuestión de la interpretación está en la voluntad de que si se quiere que se colabore o no se quiere colaborar a partir de ahí pues cada uno leerá el texto a su antojo besterik ez

original efectivamente el consejo vasco de la competencia ha emitido un informe que es lo suficientemente claro y donde se dice que el protocolo de colaboración contraviene

de defensa de la competencia esto es un hecho evidentemente claro

podría perfectamente suprimirse si efectivamente y en este caso el gobierno además no va a hacer caso a los informes de este órgano nuestra conclusión es que este consejo vasco de la competencia está demás y por lo tanto hay que suprimirlo y nosotros vamos a proceder una iniciativa en ese sentido que se suprima cuanto antes que es absolutamente innecesario ya nos parecía innecesario antes y ahora nos lo parece más emite un informe que el gobierno obvia por lo tanto para qué está
este consejo absolutamente para nada gracias eskerrik asko maneiro jauna eta amaitzeko

ruiz andrea zurea da hitza sí gracias señora presidenta mire si la esencia del protocolo

ahí sí que queda de manifiesto lo que se pretende con este protocolo porque defender la colaboración la cooperación eso suena muy bien y nadie se puede oponer a eso pero realmente lo que está buscando este protocolo en la que se ha extralimitado el gobierno a sabiendas es buscar un marco autónomo independiente

y para aprender de otros puertos sin con ello dejar de competir existe de hecho bilbao y su ciudad presidido durante años la principal asociación internacional de villas y puertos que existe

y también se ha colaborado con otros puertos a nivel internacional cosa que nos ha venido muy bien pero este protocolo es otra historia y el informe de la autoridad vasca a la competencia lo deja tan claro

señora presidenta buenos días señor consejero

con el objeto de la iniciativa que el grupo popular presenta en relación con los servicios sociales residenciales para la tercera edad y el decreto regulador la resolución

de once de julio de dos mil catorce concluye su actuación en el expediente

con relación al fallecimiento por precipitación de su madre persona mayor atendida en un centro residencial y además recomienda a la administración foral la adopción de una serie de medidas bien ahí está claro

y la resolución está claro que el ararteko

realizar una serie de actuaciones que se redactan en la recomendación en concreto el ararteko dice en el punto ocho

evidencia la conveniencia de abordar una actualización de los contenidos del decreto cuarenta y uno barra mil novecientos noventa y ocho de diez de marzo sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad mediante una modificación normativa

de atención individualizada y una adecuada tipología de los servicios todo ello

con los preceptos de la ley doce barra dos mil ocho de cinco de diciembre de servicios sociales y de su

del ararteko tienen un afán constructivo de mejorar

en relación con los servicios sociales esenciales para la tercera edad en este caso

de lo que son antecedentes consideraciones y fundamentos conclusiones y recomendaciones en el extenso informe y la extensa resolución del

a esa conclusión nosotros también hemos tramitado una iniciativa parlamentaria en forma

el criterio también del gobierno será el avanzar en ese sentido

denunciaba ante el ararteko la falta de respuesta del departamento de acción social de la diputación foral de bizkaia a la solicitud que con fecha tres de mayo de dos mil diez le había trasladado a dicho departamento con relación a la necesidad de depurar responsabilidades

injustificada de los servicios de inspección en relación con las circunstancias que rodearon un trágico suceso en la madrugada en un centro residencial de bizkaia y que tuvo como resultado el fallecimiento de la madre del reclamante

denunciaba también otras cuestiones que en la inspección realizada al centro residencial el quince de noviembre poco antes de producirse el óbito

lo que en su opinión constituían múltiples deficiencias con relación a los

problemas problemas de inspección problemas de comunicación también

con el reclamante y bueno en ese sentido

un exhaustivo análisis de la circunstancia que propicio la queja y lo que ocurrió y lo que es necesario revisar en cuanto procedimientos en cuanto a necesidades de inspección cumplimientos determinados requisitos

como cuestión puntual pero grave gravísima y que requiere un análisis y eso es lo que se trata de hacer en las consideraciones donde se constatan esas disfunciones esos defectos o fallos entre otros de inspección y la comunicación y en las

se puede incidir porque está claro que es dónde determinadas cuestiones entre otras la que se debió dar respuesta expresa y motivada a la solicitud del reclamante se debió informar al interesado en un plazo razonable de cuestiones que afectaban a la inspección se debió haberse

en una serie de cuestiones que se especifican las necesidades que los servicios de inspección analicen el cumplimiento de todos los requisitos todos

en sus inspecciones anuales recomendar a los servicios de inspección que hagan mayor uso de su potestad para incluir en sus informes aquellos aspectos que

se consideran manifiestamente mejorables es decir estamos ante una actuación del ararteko como

que da unas pautas después de un análisis concreto de una serie de disfunciones el análisis de la presente queja dice el ararteko ha permitido identificar una serie de medidas adecuadas para

la calidad de la atención en los centros residenciales bien ese es el objeto de nuestra iniciativa habiendo leído atentamente la resolución del nuestro defensor del pueblo y en ese sentido

que hacía la del texto inicial de nuestro grupo y las enmiendas que se han presentado en relación con darle trabajo al señor aburto y darle trabajo al gobierno en relación con

a que en coordinación con las diputaciones forales y eudel y de conformidad con la resolución del ararteko actualice el decreto cuarenta y uno barra mil novecientos noventa y ocho sobre los servicios sociales

acordes con las necesidades de atención individualizada y adecuada tipología de los servicios todo ello en coherencia con los preceptos de la ley doce barra dos mil ocho de cinco de diciembre de servicios sociales y su desarrollo normativo

alguien lo puede hablar que sea de carácter general que de margen al gobierno bueno no está mal si lo utiliza bien si responde a esas necesidades de mejora

cuestiones puntuales y requisitos en la prestación de los servicios sociales residenciales para la tercera edad y entendemos que es un acuerdo positivo y

amplio no se si unánime hemos firmado la transaccional estamos de acuerdo con los planteamientos recogidos en esa transaccional y con los argumentos planteados por el señor barrio votaremos a favor

no de ley radica en una denuncia ciudadana

por omisión en la inspección ante la denuncia interpuesta por el fallecimiento

en circunstancias trágicas en un centro residencial el grupo socialista vamos a votar a favor de la enmienda transada con el grupo popular vasco con el grupo nacionalistas y con upyd porque recoge la esencia de lo que planteamos en nuestra propia enmienda

quiero decir que en la respuesta que el departamento de empleo y políticas sociales dio recientemente a este parlamento ya reconoce la necesidad de dicha modificación normativa

predisposición también por parte de las diputaciones forales y de eudel para trabajar en esta modificación conjuntamente con el gobierno vasco y tratar de conseguir esa atención sanitaria que sea integral y centrada en la persona y fija como objetivo la mejora continua de la gestión de los procesos y de la calidad asistencial en atención a las personas mayores en las residencias matizar que

dice que compete a las diputaciones forales del territorio histórico donde estén ubicadas

inspeccionar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de servicios sociales en dichos centros y verificar el cumplimiento de los requisitos materiales y funcionales que están establecidos legalmente para cada servicio y para cada centro así como de elaborar los informes correspondientes a cada inspección realizada

si los hubiera así como fijar los plazos para su cumplimiento asimismo el decreto cuarenta barra mil

de nuestra comunidad autónoma establece también en su artículo cincuenta punto uno que todos los servicios y centros registrados serán

una vez al año y que en caso de que exista una denuncia la posibilidad de la actuación inspectora puede ser total o parcial a fin de esclarecer la causa de la denuncia y ahí es en lo que tenemos que basarnos mostrar

bastante antes de que el ararteko dictara su resolución ya venía trabajando en la mejora del decreto cuarenta y uno barra mil novecientos noventa y ocho

la viceconsejería de políticas sociales del gobierno vasco miembros de los servicios de inspección de las tres diputaciones forales y eudel

que fue aprobado y en cambio proceder a sustituirlo

uno sobre centros residenciales para personas mayores y otro de servicios de alojamiento para personas mayores se crearon dos grupos de trabajo uno por cada decreto con representantes de los tres ámbitos institucionales del país que han ido avanzando en los contenidos de cada decreto azpimarratzekoa da

por lo tanto señor barrio el gobierno vasco junto a las tres diputaciones forales y eudel ya está trabajando en la actualización del decreto cuarenta y uno barra noventa y ocho

respuesta que además le fue remitida por escrito se está trabajando para introducir que el modelo de atención de las residencias para personas mayores tenga como objetivo básico

de modo que redunde en la mejora de la calidad de vida de las personas usuarias además se determinarán las actuaciones necesarias para promover la mejora continua de la calidad

así como desarrollo de medidas para la mejora del funcionamiento del servicio por eso presentamos nuestra enmienda instando al gobierno a continuar en colaboración con las diputaciones y eudel con los trabajos de sustitución del decreto porque ya se venía haciendo

dicha labor como ya hemos repetido en muchas ocasiones todo lo que suponga mejorar el funcionamiento del servicio en este caso de las residencias para personas mayores bienvenido sea puesto que redundará en beneficio de las personas usuarias del servicio las enmiendas presentadas por todos los grupos son muy similares porque

a la firma de la enmienda transaccional que como ya han leído ustedes pues no la voy a repetir

finalicen cuanto antes y se traigan aquí los dos decretos se

barrio jauna zurea da hitza sí muchas gracias señora presidenta con su permiso desde el escaño

estaremos ahora atentos a no hemos puesto plazo en relación con lo que es la proposición no de ley en relación con el trabajo del gobierno estaremos atentos a la redacción de esos decretos y agradecer a todos los grupos parlamentarios el apoyo a la enmienda definitiva muchas gracias